josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

y vuelta la burra al trigo pero no lo voy a decir por si se malinterpreta ezetz eta ezetz esan zigun

nabarmenki igoz una de las alegaciones presentadas al proyecto de decreto por el tercer sector social realizaba la siguiente advertencia sobre el decreto corremos el riesgo de tener residencias arquitectónicamente maravillosas

la calidad asistencial recursos humanos

hemeretzi ordutara mugatuko litzateke un decreto que literalmente

adolece de múltiples incongruencias e incoherencias de hecho la comisión jurídica asesora de euskadi trata en su dictamen de literalmente desentrañar

queda definido de esta manera por el tercer sector social un borrador con mucha letra exactamente

pero con un contenido más que discutible en aspectos fundamentales sensibilidad real de la ratios de personal a los perfiles de los residentes es decir

mientras se reduce el tiempo de atención y señoras y señores parlamentarios con caracteres de texto no se atiende a las personas residentes sino con horas de cuidado

ya en dos mil catorce el ararteko en el informe presentado ante el parlamento vasco

que lo que plantea es utilizar un baremo muy similar que se utiliza para medir la discapacidad

y qué propone propone setecientos ochenta horas anuales de atención directa en centros por cada mayor dependiente setecientos ochenta

década de los noventa finales de la década de los noventa b atalean arartekoaren ebazpena aintzat hartuz ratioak zuzeneko harretako pertsonaren presentziaren arabera

esta fórmula en esta fórmula el problema que encontramos

anual del convenio laboral y esto conlleva que la atención directa que reciben los residentes dependa

correspondiente esta fórmula de cálculo genera monstruos por ejemplo

el centro puede funcionar automáticamente con menos personal incrementando la carga de trabajo diario de las auxiliares de geriatría en analogía por ejemplo a la trampa de la pobreza

como una trampa de la precariedad porque constituye un mecanismo automantenido que provoca que la precariedad persista en el sector utilicemos otro ejemplo para ilustrar

en relación a los tiempos de cuidados de las personas dependientes por ejemplo

está previsto una reducción de la jornada laboral entre el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós bien esa reducción de la jornada laboral ya acordada en ese convenio

por mor de esta fórmula una reducción de casi dos minutos de atención diaria para una persona con dependencia severa o gran dependencia combatir esos monstruos supone como proponía el ararteko en su resolución establecer ratios de presencia física del personal de atención directa

eta arreta mota hartzea aintzat al igual que hacía el decreto anterior ya hace veinte años la ratio del nuevo decreto vuelve a organizarse en dos únicos perfiles de personas usuarias

el tercer sector social manifestaba lo siguiente negar los perfiles atendidos

sería una osadía cuando no una desconexión total con la actual configuración de las residencias desconexión

equiparar las necesidades de atención del grado cero y del grado uno

como se ha manifestado durante la tramitación del decreto un error de partida cuando no un absurdo empírico de hecho

las necesidades asistenciales de estos grados son objetivamente diferentes entendemos que salvo que exista una justificación que debía conocerse y que a día de hoy nadie conoce ambas categorías deberían de tratarse separadamente según su propia diferencia a esto el departamento responde y responde lo siguiente las necesidades de las personas con riesgo de dependencia y las de dependencia modera son parecidas

ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día

esta descripción es precisamente la que define a un dependiente moderado

es que en realidad son dependientes moderados miren soy un gran aficionado a la física quántica

estados al mismo tiempo si examinamos el conjunto de la producción legislativa del departamento de empleo y políticas sociales

pero dependientes moderados que en realidad no son dependientes de acuerdo con el proyecto para la ley

familiar y laboral todo esto sería realmente cómico sino fuera trágico puesto que la atención que recibirá un dependiente moderado se va a recudir en casi treinta

beti ere salbuespenak arautuz oinarri egokiarekin porque se nos decía decía al principio serán arquitectónicamente maravillosos los centros residenciales de personas mayores bueno vimos una portada nada más aprobar el decreto que decía el setenta y cinco por ciento de las plazas residenciales vascas deberán ser individuales en dos años esta portada pudimos leer

no deberán cumplir ninguno de los nuevos requisitos materiales ninguno una vez más el departamento de empleo y políticas sociales primero prensa y después piensa

el capítulo segundo relativo a los requisitos materiales recurre

por ejemplo en la exposición de motivos del decreto se recoge literalmente que la disposición adicional

hay una excepción de su aplicación para los centros experimentales en cambio vamos a la citada disposición y ahí se habla solo de la acreditación de los centros

de esta contradicción ya fue advertido el departamento por la letrada de la dirección de servicios dos años antes de su aprobación y más tarde la cojua hizo la misma advertencia

pero tres artículos más tarde se recoge que las áreas comunes en los centros de menos de veinticinco plazas tienen que tener determinado tamaño deben tenerlo o no deben tenerlo

cuestión que la cojua dice que es la más problemática del decreto puesto que su dictamen recoge

y proporcionada pero que plantean que no observa con idéntica claridad una justificación para excepcionar

por ejemplo condiciones de habitabilidad comunión seguridad protección y accesibilidad

no quisiera terminar sin mencionar una cuestión que me ocurrió el pasado sábado

la euskadi sostenible por un nuevo pacto intergeneracional para un país de cuidados y ahí había representantes de todo el arco parlamentario joseba estaba borja estaba también un compañero de podemos estaba allí y había representantes

este documento recoge lo siguiente si el cuidado forma parte natural de la vida del ser humano

los desafíos que plantea el envejecimiento tendrían que ser considerados como un incentivo para progresar como sociedad para demostrarnos a nosotros y nosotras mismas que podemos lidiar con ello apuntalando nuestro modelo de bienestar con una promoción de un pacto social que construya un puente sólido y duradero entre generaciones

es que las generaciones que formamos parte de este parlamento garantizarnos un cuidado digno a aquellas generaciones que actualmente están siendo
atendidas en residencias de personas mayores en los tres herrialdes eskerrik asko eskerrik asko

eta ematen du gauzak espero ziren bezala ez direla egin han transcurrido más de diez años de la aprobación de la ley de servicios sociales y más de tres años desde la aprobación del decreto de cartera que regula los servicios

del sistema vasco de servicios sociales entre ellos los centros residenciales como todos sabemos la ley de servicios sociales marcó un hito configurando como derecho

y servicios recogidos en la citada ley está claro y hay que darle un tirón de orejas y este grupo así lo ha hecho en reiteradas ocasiones a este gobierno al gobierno vasco

años por el escaso desarrollo reglamentario de este decreto y que también los decretos hayan llegado tarde y una vez también que han llegado

decreto que no ha cubierto todas las expectativas que se habían generado en torno al mismo el objetivo

creo que estaban absolutamente justificados aquellos mandatos en los que requeríamos al gobierno vasco la actualización de

al gobierno vasco ha habido que tirarle de las orejas varias veces porque parece ser como suele ser bastante habitual

hizo caso omiso en un primer momento a los mandatos de este parlamento

y la asistencia personal necesarias beharrezko arreta eman behar zaio

también hay que intentar que esa atención integral garantizando a las personas

personal del desarrollo personal como decía este decreto que

este mes de septiembre se aprobó en julio y se publicó en septiembre está claro que no ha cumplido todas las expectativas sí que es cierto que desde este grupo tampoco nos planteamos

se contemplan en el decreto pero sí que es cierto que como se ha dicho aquí

que específicamente se contenían en un informe de la asesoría jurídica del propio departamento como en los dictámenes de la comisión jurídica asesora y del propio

que no establece unos objetivos demasiado ambiciosos por ejemplo cuando hablamos de los ratios de atención hay ratios que ya se fijan y que algunas

superan esas previsiones obviamente sí que es cierto que el gobierno vasco al establecer un marco regulador de esta materia en el citado decreto establece un mínimo que es cierto también que las diputaciones forales pueden ampliar

de los aspectos y en ese sentido pues como decía no se han cubierto todas las expectativas cuando este decreto además tenía

sin ninguna duda a uno de los retos principales que tenemos como sociedad y es algo que el

parece ser que el gobierno vasco este gobierno no se toma demasiado en serio el reto demográfico el desafío demográfico que tenemos con las bajas tasas de natalidad que también

comparativamente con el resto de españa sino con europa y también lo que es el envejecimiento progresivo de la población

hemos analizado de forma exhaustiva la propuesta inicial de bildu

creo y en ese sentido nosotros planteamos nuestra enmienda de transacción creemos señor rodríguez que es mucho más correcto hablar de revisión del decreto ustedes inicialmente hablaban de suspender el decreto cosa que no cabe la suspensión y menos desde el departamento decretar o instar al gobierno

una disposición normativa o una ley o un decreto pero ustedes al final han mandado una corrección diciendo que querían decir derogar

de un decreto pero nosotros entendemos que es más correcto y dado que si derogamos

el del año noventa y ocho no entraría automáticamente en el año noventa y ocho y a nosotros obviamente se nos plantea la duda de que se generaría una enorme incertidumbre en el sector y en aquellas personas

montar una residencia o adaptarse a la normativa vigente no sabríamos qué normativa habría que aplicar y por lo tanto qué contenidos específicos de regulación habría en esta materia

en ese sentido también apelo al grupo proponente el grupo

elkarrekin podemos no va a presentar enmienda y sí que tengo que decir que la enmienda del partido nacionalista vasco tampoco viene a decir mucho más bien dice nada viene a decir que se continúe con la línea cuando ya digo que algunos aspectos de este decreto creo

mejorar sustancialmente atendiendo a las previsiones como digo de algunos de los documentos e informes que se han elaborado en toda la tramitación de este

teniendo en cuenta los documentos a los que he hecho referencia y que se modifiquen aquellos aspectos del nuevo decreto necesarios para proporcionar una atención adecuada entre los que consideramos que hay que incluir los siguientes establecer ratios de personal adecuados diferenciando los niveles de dependencia

creo que en esta cuestión se puede avanzar más y se puede quedar más clarificada

sería una de las cuestiones que habría que modificar en esa supuesta revisión atender a la tipología naturaleza y tamaño de los diferentes centros residenciales

que la hemos puesto desde el grupo popular en reiteradas ocasiones encima de la mesa es decir

absoluta para todos los centros residenciales y creo que es necesario establecer

todo el mundo entendemos que son distintos

de psicogeriatría unidad sociosanitaria o la unidad de convivencia y por último

a propósito de todos los debates y tuvimos también ocasión de participar como grupo en unas jornadas organizadas por este parlamento para hacer un balance de la ley de servicios sociales

ha sido muy escaso ha sido tarde lo que ha impedido también hacer efectivo ese derecho subjetivo que se configuraba en la propia ley pero creo que también y si somos honestos

desde una perspectiva de respeto competencial y desde una visión también

si somos honestos todos en esta cámara y coherentes deberíamos también instar a la modificación de la ley que hace el reparto de recursos en el conjunto de la comunidad autónoma que es la ley de aportaciones es decir no podemos decir a las diputaciones

previstos en el catálogo aprobado en el decreto de dos mil quince cuando luego no tienen los suficientes recursos para realizar esos contenidos que tienen encomendados por lo tanto

pero creo que es algo que también es absolutamente oportuno que se recoja

específico en nuestra enmienda de sustitución en principio tengo que decir que nos parece más correcta nuestra enmienda más exacta hablamos de revisión del decreto y de modificación del decreto en un sentido pero creemos sinceramente

normativo que no sería adecuado y generaría mucha incertidumbre y no sería bueno

no sé me puede convencer en el segundo turno pero nuestra posición es esta ya le digo que bastante trabajada además besterik gabe eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta hoy el grupo parlamentario eh bildu a través de esta iniciativa

residenciales para personas mayores en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco y que fuera sustituido por otro decreto en el plazo de

el debate de este punto nos ha llegado la corrección de errores que dice que donde

que quedara en suspenso ahora se solicita que se derogue

desde luego es más correcto pedir su derogación porque no puedes suspender un decreto y sustituirlo por otro vigente en la anterior

porque ya lo ha dicho la señora garrido nosotros también creemos que además generaría esta petición de derogación una inseguridad jurídica muy peligrosa que traería muchos perjuicios porque ya está derogado con la aprobado del anterior el decreto actual

pero no es el primer intento que se realiza por este grupo parlamentario ya debatimos en mayo de dos mil diecinueve en la comisión de empleo y políticas sociales

con la presentación de una proposición no de ley sobre volver a realizar el informe de impacto en función de género del decreto de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco

esa propuesta ni la enmienda transaccional que se presentó por el grupo eh bildu y elkarrekin podemos y además dentro de la propia iniciativa también se marcaba

y a nuestro grupo parlamentario los socialistas vascos esto nos pareció un despropósito contábamos con el informe de impacto de género

desde octubre del dos mil diecisiete pero esa iniciativa se presenta dos años después en marzo del dos mil diecinueve por el grupo eh bildu y se decía

sino dos informes de impacto de género por emakunde y el departamento de empleo y políticas sociales que no les gustaba ese informe y que se elaborara otro y además definía lo que tenía que recogerse dentro del mismo es decir

a través de su grupo si no se hace el informe en unos casos se pone de excusa

como en el caso de la renta de garantía de ingresos y si se hace se dice que no les gusta y que se repitan porque además ese informe consideran que tiene que llevar una serie de puntos

era retrasar el desarrollo del decreto de centros residenciales buscando cualquier excusa y

vuelven a pedir una vez que ya se ha aprobado el decreto de centros residenciales que se derogue el mismo evidentemente esto no nos parece serio y últimamente nos estamos acostumbrando tanto por el grupo

iniciativas idénticas o muy similares que han sido rechazadas en anteriores plenos o en las comisiones correspondientes el decreto de centros residenciales para personas mayores recientemente aprobado

que deben reunir los centros residenciales para personas mayores y establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento acreditación y homologación en su caso y supone un avance en la consolidación del sistema vasco de servicios sociales se presentó por la consejera de empleo y políticas sociales en la comisión de empleo y políticas sociales de este parlamento en el año dos mil diecisiete cumplió el mandato asumido por la pnl aprobada en febrero del dos mil diecisiete en este parlamento

cuenta con todos los informes necesarios y en el pleno del consejo vasco de servicios sociales del cinco de febrero del dos mil dieciocho se emitió informe preceptivo contando el borrador del decreto con veinte votos a favor uno en contra y dos abstenciones por lo que se aprobó por una amplia mayoría

donde tienen voz diferentes instituciones y asociaciones no se puede defender ahora su falta de consenso

del decreto así este decreto

ha contado con una amplia participación y coordinación de colegios profesionales y de asociaciones se recopiló normativa específica y se tuvo en cuenta la realidad de las tres diputaciones y supone un avance de coordinación entre instituciones

en los diferentes territorios de nuestra comunidad que había que intentar homogeneizar desde el respeto a las necesidades de carácter de la red de atención en cada

en el pleno de control del once de octubre pasado que la diputación de álava ya ha manifestado que no hay impacto alguno

son superiores a los indicados en el decreto y lo mismo en gipuzkoa donde la diputación ha señalado que los ratios de personal ya se encuentran implementados

como le indicó la consejera de empleo y políticas sociales también en el pleno de once de octubre a que el decreto fija unos requisitos que por supuesto pueden ser mejorados por las diputaciones que es lo que se da en los diferentes territorios como el señor

eso se regula en otras normas en este decreto se mejoran los ratios respecto del decreto de mil novecientos noventa y ocho y se introducen una serie de mejoras habla de una atención personalizada de enfoques de planificación centrada

mejora el porcentaje de habitaciones individuales y ha contado con un consenso institucional consensuada con las tres diputaciones con el consejo de políticas sociales en euskadi por eso no podemos apoyar la iniciativa que ha presentado hoy el grupo eh bildu porque

es la derogación de este decreto y que se elabore un nuevo decreto además dando para ello un plazo de seis meses en estos seis meses se produciría

al principio de mi intervención y además quiere que se haga con todo el consenso con toda la participación de nuevo

y se vuelva a aprobar de nuevo otro decreto y nosotros evidentemente no estamos

con lo que usted plantea y defendemos el mantenimiento

considera que tiene que llevarlo a cabo igual esta iniciativa bueno

con esta iniciativa y lo que nosotros vamos a defender

socialista donde el parlamento vasco insta al gobierno vasco que en el desempeño de sus funciones normativas y de planificación en materia del sistema vasco de servicios sociales continúe avanzando en el despliegue de la red de atención en el conjunto de euskadi de una forma que se adecúe

a la arquitectura institucional del sistema y a la autonomía de cada institución y el modelo comunitario de atención que reclama también la descentralización y

con la modificación del decreto que ha planteado el grupo popular y es por ello por lo que como he dicho vamos a defender nuestra enmienda

a eh bildu le vale cualquier crítica para poder criticar luego la acción de gobierno porque

y nos llama la atención que utilicen las alegaciones que hace el tercer sector cuando hemos visto en la diputación de gipuzkoa cómo lo que han intentado es

publicicándolo por lo tanto nos ha llamado la atención que al principio de vuestras palabras se haya puesto en valor esas alegaciones voy a ir a los datos datuetan

hobetzen duela que los centros de nueva creación deberán contar con más plazas individuales hasta un setenta y cinco por ciento en el lugar del veinticinco por ciento actual

de atención directa deberá ser superior al sesenta y cinco por ciento ahora no

de la vida diaria o personal técnico pero no el de gerencia gestión y administración que antes sí que se incluía

también con este decreto se dan mejoras en la atención farmacéutica igualmente respecto al decreto anterior se retrasa la edad necesaria para solicitar el acceso a los sesenta y cinco años

el acceso de los cónyuges o parejas de hecho de las personas usarías así como de quienes acrediten tener

con ella una relación de convivencia habitual en este nuevo decreto también buscando

y dar una atención más personalizada el nuevo decreto acota el tamaño de los centros residenciales estableciendo una capacidad máxima de ciento cincuenta plazas por centro y establece una estructura modular con un máximo de veinticinco plazas por módulo

que recoge este decreto que desde luego pensamos que son muy importantes para la mejora de la calidad del servicio que se presta

creemos que este decreto buscaba un objetivo claro que es garantizar un mayor bienestar y una correcta atención a las personas mayores dándoles a las personas los cuidados y asistencia personal necesaria que las personas usuarias mantengan sus relaciones con el entorno comunitario y llamarles a participar en ese mismo y favorecer su sentimiento de seguridad asimismo se define que el modelo de atención será integral y centrado en la persona

en ese marco se define un plan integral de atención donde la participación de la propia persona usuaria y su familia serán fundamentales por lo tanto

este pasado mes de julio este pasado verano de centros residenciales para personas mayores un decreto que en nuestra opinión viene tarde y viene mal viene tarde porque ya se ha dicho los centros residenciales estaban regulados mediante un decreto del año noventa y ocho a pesar de algunas pequeñas modificaciones del año dos mil cinco y dos mil seis un decreto por lo tanto en buena medida había quedado obsoleto en nuestra opinión obsoleto no tanto por lo viejo de aquel decreto es decir por la edad que tiene aquel sino porque ha cambiado la realidad de aquello que regula y por lo tanto si no adaptamos la regulación a la realidad la regulación no es eficaz eso es cierto y además ser eficaces en esta cuestión a la hora de regular los centros residenciales para las personas mayores

o no por lo tanto es una cuestión importante sobre la que en nuestra opinión el gobierno no debería haber dejado pasar tanto tiempo en ningún caso

consecuencias que afectan de una manera determinante a la vida

en las residencias estas se han visto perjudicadas por esta falta de acción del gobierno vasco y más concretamente en este último periodo del departamento de empleo y políticas sociales pero el problema para nosotros no es tanto que venga tarde

es que viene mal viene mal porque su contenido no va a dar solución a los principales problemas existentes en nuestro modelo de centros residenciales para personas mayores

no son las mejores posibles con los recursos de los que disponemos en la comunidad autónoma no son las mejores condiciones

en el decreto respecto a lo que teníamos anteriormente pensamos también que esto no es mucho mérito porque el anterior decreto como hemos dicho tiene más de veinte años es difícil

algún elemento pero también hay que decir que estas pequeñas mejoras que puede contener el decreto tienen que ver sobre todo con las infraestructuras que deberán tener las residencias y en muchos aspectos solo atañe a las nuevas residencias ya lo he explicado perfectamente creo el señor

es que son varios los elementos que van a empeorar con el nuevo decreto y que van a afectar a las personas mayores en las residencias de una manera negativa y sobre todo que las cuestiones fundamentales algunas de las más importantes

la calidad de vida de las personas mayores en estos centros no son mejoradas con el decreto y no van a resolver los problemas existentes al contrario aunque el gobierno

que van a mejorar la situación van a empeorar la situación de estas personas en los centros residenciales esta es la razón por la que nuestra coalición va a respaldar

suspender o derogar un mal decreto para plantear un decreto que sí contenga

es un buen planteamiento que vamos a respaldar una de las cuestiones fundamentales en nuestra opinión para abordar la regulación de las residencias de mayores

que el señor rodriguez ha llamado recursos humanos

las trabajadoras de las residencias mayoritariamente mujeres si a estas alturas

de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras de manera especial en lo que tiene que ver con las cargas y ritmos de trabajo es algo absolutamente necesario para poder garantizar la calidad en estos servicios públicos a las personas mayores es que no ha comprendido nada o que lo ha comprendido todo pero que simplemente quiere ahorrar dinero

mayores en el centro a la hora de gestionar no es solo que sea justo mejorar las condiciones de trabajo de estas trabajadoras

es necesario si queremos que haya una buena atención en las residencias los convenios colectivos regularán sus condiciones de trabajo las que puedan conquistar en la negociación los sindicatos pero el decreto este decreto como tantos otros recoge cosas que afectan a esas condiciones de trabajo

esas condiciones de trabajo son determinantes para la buena mala o regular atención que les demos a las personas mayores en los centros residenciales

son conflictos que se producen como consecuencia de una realidad muy concreta

las condiciones laborales de los trabajadores de residencias no son buenas no lo son en líneas generales en ninguno de los tres territorios aunque haya diferencias entre ellos

repercute de una manera directa de una manera determinante en las condiciones de vida de las personas mayores en las residencias

cualquiera que tenga en su entorno a una mujer trabajadora en residencias de mayores sabe cómo andan con una carga de trabajo enorme con prisas turnos cambiantes parcialidad excesiva calendarios muchas veces incompatibles con la conciliación no poder planificar ni sus vacaciones las condiciones actuales no garantizan la adecuada atención a las personas en las residencias y el nuevo decreto no puede solucionar esta cuestión en los términos en los que ha sido aprobado más bien al contrario puede empeorar la situación

va a suponer de hecho menos horas de atención a las personas mayores en las residencias menos horas de atención a personas que necesitan esa atención con diversos grados de dependencia para nosotros la conclusión es clara el decreto en los términos en los que está planteado y desgraciadamente aprobado ya por el gobierno

es un mal decreto con consecuencias negativas para las personas mayores en las residencias y para las trabajadoras de las mismas dichas las razones por las que vamos a respaldar la moción que trae el grupo eh bildu hoy

más de fondo sobre el modelo que tenemos para las residencias de mayores tenemos un modelo como en otros ámbitos en nuestra opinión excesivamente volcado en lo privado la mayoría de plazas residenciales en nuestra comunidad son privadas concertadas

tenemos más del doble de plazas en residencias privadas que en residencias públicas algo que no es casual sino que es producto del modelo que se ha decidido impulsar en el tiempo es un modelo que nosotros no compartimos aun reconociendo que una parte de la concertación

para nosotros la atención a las personas mayores debería contar con una red de centros residenciales públicos capaces de dar cobertura a la demanda existente

y sabemos que eso cuesta mucho dinero pero tampoco nos chupamos el dedo el actual modelo no se ha construido tampoco de la noche el sistema que construyamos depende del modelo que queramos impulsar e implantar el modelo basado en un peso importante de las empresas privadas supone un mayor coste a la larga para la administración pública y supone siempre mayores dificultades para garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector

también mayores dificultades para conseguir unas buenas condiciones a las personas mayores en las residencias si no hay beneficios el negocio no interesa esto es lógico por lo tanto para que las residencias privadas funcionen necesitan garantizar

necesitan el reparto de ciertos dividendos esto es así y por lo tanto hay una parte de capital que acaba en los bolsillos de alguien esto

eso es así también en muchas empresas del tercer sector aunque haya fórmulas también para ocultarlo y en cambio una residencia pública no debería ser deficitaria pero no necesita tener

y ese capital de existir se puede quedar en el sistema público nosotros pensamos que un modelo basado en la propiedad pública es un modelo mejor para garantizar la calidad de atención

y para garantizar que las condiciones laborales de las trabajadoras sean las adecuadas precisamente para garantizar esa atención porque desde luego debemos

servicio público hecha esta reflexión algo más de fondo sobre el modelo que no queríamos dejar pasar la ocasión reiteramos nuestro apoyo a la moción

a las personas mayores en las residencias el contenido de la moción mejora sin lugar a dudas el decreto existente y aprobado en estos momentos

bueno voy a comenzar con los grupos que sustentan al gobierno con unos comentarios que han hecho

ha reconocido usted que yo tenía razón y que el impacto es nulo

es nulo muy bien esto es un problema es un problema porque usted forma parte de un grupo que apoya al gobierno y deja a los pies de los caballos a la consejera que dijo literalmente que este decreto mejoraba el cuidado de nuestros mayores pero que venga usted y diga aquí

entre ustedes a la representante del pnv hay un problema que es repetir como un loro lo que alguien le ha dicho sobre el tercer sector social

que ha articulado como campaña política markel olano contra euskal herria bildu

tres apuntes solo primero sobre la relación con el tercer sector social es el pnv el que ha expulsado a la cruz roja de la prestación del servicio de playas de gipuzkoa cruz roja tercer sector social segundo por ejemplo el modelo de atención a la discapacidad

es un modelo construido entre el tercer sector social de gipuzkoa y la diputación foral de gipuzkoa entonces en manos de euskal herria bildu y otro ejemplo le voy a dar en nuestro grupo parlamentario hay personas procedentes

también encontrará a personas procedentes del tercer sector social por lo tanto

que cuestione la relación que tiene euskal herria bildu con no es que no se lo permito

habla de participación y habla de que es un trabajo que ha costado mucho tiempo bueno yo creo que ha sido en parte para salir del paso pero

que el decreto es un poco para salir del paso porque dice literalmente de hecho la cojua

al texto articulado el contenido de los anexos del decreto cuarenta y uno barra noventa y ocho no realizándose todas las adaptaciones que requería esa traslación buena muestra de ello es la titulación de los párrafos los párrafos deben fijar una idea en una oración completa cosa que no sucede en el artículo

no ha habido pasando a la cuestión que trasladaban sobre deroga o revisar decreto primero esto al señor arbulo se va gustar

han hablado del decreto del noventa y ocho como un decreto derogado pero es que no está derogado está solo parcialmente derogado parcialmente derogado de hecho la cojua decía al respecto por lo que se refiere a la fórmula escogida la comisión considera más acertado aprobar una norma completa que regule el régimen de los centros residenciales para personas mayores

a lo que el departamento respondía literalmente es que es complicado complicado después de cinco años es complicado pero bueno teniendo que decreto del noventa y ocho está parcialmente en vigor

por seguridad primero se lo voy a intentar exponer desde el punto de vista

desde el punto de vista de alguien que ha asumido la gestión de

en primer lugar si solo instamos a la revisión sobre todo sin establecer un marco temporal

para ir adaptándose a los nuevos requisitos funcionales materiales y personales no van a saber qué hacer porque estarán pensando vale yo tengo un mandato de este decreto pero por lo mismo

pero se lo voy a decir también yo como experiencia como exdiputado preferiría que se me dijera claramente miren queda derogado este decreto

que derogado el decreto derogado ese decreto al mismo tiempo se diga y

en tanto en cuanto se esté revisando el texto

inseguridad jurídica pero termino creo que su propuesta es una reelaboración de nuestra propuesta sinceramente lamentablemente solo he tenido que certificar

desde euskal herria bildu defendemos que el cuidado de las personas debe elevarse a categoría política el cuidar

y actuaremos en consecuencia comparto quiero compartir una última reflexión con usted

el árbol de pesares no nos debe impedir ver el bosque eskerrik asko eskerrik asko

todos sabemos que el anterior decreto vigente hasta que se ha derogado en muchos de esos aspectos por el actual publicado en septiembre

los decretos en vigor se pueden revisar y se pueden modificar por lo tanto ahí no veo mayor problema

desde luego como decía el portavoz de podemos pues para unos este decreto será mejor para otros no quizás para ustedes es todo derogable

en una posición tan extrema creemos que algunos aspectos de este decreto sí pueden estar bien pero otros no y en ese sentido pues hemos planteado su revisión y en su caso su modificación claro también aquí

para hablar y para mezclar cuestiones laborales que creo que ese es otro tema y que desde luego

tienen su importancia pero no parten de exactamente de algunos aspectos que se puedan contener en la regulación

ámbito de las empresas específicas que prestan este servicio

jurídico creo que es más correcto entendemos que es más correcto

hablar de revisión y de modificación del mismo como se hizo en el año noventa y ocho en el año dos mil cinco y el dos mil seis se pondrían parches lo que queramos

en sucesivos mandatos que se actualizaran los decretos correspondientes entre ellos el de centros residenciales pero se fue tirando de ese decreto haciendo modificaciones yo creo que una vez que ahora que tenemos un decreto en vigor que ya está en vigor que ya es de aplicación es que ya está de aplicación es que ya se está aplicando este decreto es que no es un decreto

que no haya entrado porque ustedes también podrían haber presentado una iniciativa en este parlamento pidiendo

de características pero es que este decreto ya está en vigor por lo tanto es el marco jurídico y el marco normativo al que se van a atender los centros residenciales

que están en funcionamiento con los periodos de adaptación correspondientes que también usted sabe como yo que también en algunas cuestiones los informes

pero es el que tenemos actualmente en vigor por eso nosotros entendemos que lo mejor claro porque la derogación automáticamente

automáticamente usted no lo dice en su iniciativa usted dice se deroga el decreto en vigor pero no se dice automáticamente que entra

que sí habría un vacío normativo y que en ese sentido pues es más exacta nuestra redacción al hablar de revisión y de modificación le invito también a que pueda

nuestra iniciativa pero creo que sinceramente es más correcta los términos

a la hora de plantear una revisión de un decreto

toda la tramitación del decreto y por otra parte algunos aspectos concretos en cuanto a las ratios tipologías de residencias todo lo que tiene que ver con unidades psicogeriátricas y socio sanitarias que obviamente creemos

de lo que ha ido el propio decreto y también además son aspectos como usted bien sabe que además me consta que el tema se lo ha trabajado hace referencia en los sucesivos informes y contenidos por lo tanto obviamente mantendremos nuestra iniciativa por ser más

es que había que adaptar el decreto a las nuevas realidades y es lo que se ha efectuado

trabajo de participación después de contar con un consenso importante

votación en una amplia mayoría a favor de dicho decreto y contar con todos los informes necesarios para ello

usted no ha escuchado bien mis palabras y las ha cambiado no no las ha escuchado porque cuando usted ha dicho que

a la consejera de empleo y políticas sociales porque he dicho que el impacto del decreto es nulo yo no he dicho eso yo he dicho que el impacto de los ratios es nulo porque

superados y que usted mismo en su primera intervención ya reconoció que estaban superados en los distintos territorios y no

estamos por encima con lo cual estamos muchísimo mejor entonces no es correcto lo que ha dicho usted yo me he referido a otra cosa completamente distinta y en su primera intervención señor rodriguez usted hacía referencia

o le extrañaba que en el tema de los requisitos estructurales que

y desde luego no se puede pedir a los centros existentes en la actualidad

los requisitos que ahora se recogen en el nuevo decreto porque eso generaría también un caos es lógico que se pida

sean las que tengan que cumplir los requisitos que ahora mismo están recogidos y que varían

anterior no podemos entrar en la no regulación usted sabe perfectamente que la gran mayoría de este decreto sería derogada y entraríamos en un caos jurídico durante un montón de tiempo eso es lo que quiere para los centros residenciales de personas mayores el caos jurídico que se alargue durante cuánto tiempo porque usted dice no que se hagan seis meses pero ahora quiere que se haga con consenso que se haga con un mogollón de participación que se elabore otro y que se tenga todo hecho

si quiere hacerlo como usted dice que se tiene que hacer con lo cual no proponga la generación del caos

que las personas en los centros residenciales tengan que estar en un caos jurídico hasta que se tenga que aprobar lo que usted considera que además aunque se apruebe otro a lo mejor tampoco le gusta y querrá que se cambie otra vez porque es lo que estamos acostumbrados últimamente a que pidan continuamente se aprueba una cosa no me gusta que se cambie que se anule la aplicación de ese decreto etcétera etcétera

lo que quería votar el grupo elkarrekin podemos suponíamos que el señor hernández apoyaría la iniciativa del grupo eh bildu lo ha hecho usted ha propuesto que le usted

aunque eso suponga un caos jurídico a ustedes les da igual pasaríamos al caos jurídico hasta que se aprobara otra vez un nuevo decreto nosotros votaremos por supuesto en contra de la iniciativa

y de la propuesta de ese caos jurídico desde luego evidentemente en todo caso es más correcto hablar de una modificación

propuesta efectuada por el grupo popular por eso

es apoyar la enmienda a la totalidad que hemos presentado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista porque es la única
coherente nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

eskerrik asko presidente andrea señor rodriguez eso de que no me permite yo diré en esta tribuna lo que crea oportuno y conveniente en el debate que tengamos

más que tirar de hemeroteca cualquiera de nosotros para saber cuál era el modelo que se buscaba en los cuatro años de gestión

de gipuzkoa por lo tanto no creo que deba ni siquiera molestarse al escuchar

buscabais era la publificación de los servicios y ahora utilizar eso

poco coherente ya es tampoco voy a entrar en ese debate de quién es más experto en este

más científicos o menos no voy a entrar en eso yo creo que aquí venimos a hacer política y a marcar unas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país y a eso nos tenemos que adecuar no voy a entrar en ese debate de quién es el experto

creo que en este debate también deberíamos de tener en cuenta cuáles son qué es lo que piensan los usuarios de estos servicios y sus familias y vemos que cuando hacemos encuestas sobre cuáles son esa bueno qué es lo que piensan

a las personas residentes en residencias y creemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de estos servicios y para mejorar todavía más esa atención cada vez más personalizada

desde las residencias eso no lo vamos a dejar de lado pero creemos que partimos de una buena situación azken batean dekretu honekin eta baita martxan jartzen diren beste hainbat

un caos señora sánchez es que una persona mayor dependiente

sea atendida solamente durante siete minutos al día eso es un caos

una moción en este caso no solo no supondría

reconozca usted al menos que sería un caos producido por la mayoría

porque hace falta algo más que el voto de la coalición elkarrekin podemos que parece usted que nos acusa de haber venido aquí a generar el caos porque sí ustedes se han agarrado a una cuestión técnica

ustedes saben cuál es la intención de la iniciativa el texto puede poner lo que quiera es una moción luego el gobierno va a hacer también lo que quiera

el debate no son los términos exactos en los que se redacta una moción el debate

el decreto va a suponer una mejora en la atención a las personas mayores en las residencias o no nosotros décimos que no decimos que no desde hace varios meses desde que salió el decreto y por lo tanto por eso

esa moción el decreto regula cosas que afectan de manera muy determinante a las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sector siempre se me dice aquí no es que estamos hablando de otra cosa y usted ya está con las condiciones de trabajo el decreto regula cosas que son determinantes para las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo son determinantes para la atención que tienen que recibir las personas mayores en las residencias y por eso discutimos de esta cuestión

a los grupos que apoyan al gobierno parece que dicen eso de las condiciones de trabajo es otra cuestión eso ya lo hablarán allí los sindicatos y las empresas privadas muchas pues resulta que en el decreto

características del centro podrán ser a tiempo parcial pues para qué recogen ustedes

podían no poner nada la parcialidad o no de las jornadas ya la negociarán también

ustedes sí lo ponen porque saben que feminizado tiene un exceso un abuso de parcialidad en las jornadas entonces para algunas cosas sí y para otras no nosotros vamos a votar a favor de la moción nos parece que el decreto no es acertado no es una cuestión jurídica sobre si está mejor o peor redactada

es una cuestión de voluntad de si se quiere que este decreto sea el que se aplique o

para que el decreto recoja una serie de cuestiones diferentes para garantizar unos ratios más adecuados que permitan que las personas mayores en las residencias

decía que no sabemos cuáles eran las características

que saldrá a raíz del acuerdo al que hemos llegado hoy

hace unas semanas cuando acudimos la comisión de educación a las jornadas gozo de alimentación escolar saludable y sostenible

me quedó la sensación de que sí o sí en este país nos merecemos un sistema de comedores mejor

y un sistema de comedores más similar al que podemos ver en otros sitios

por eso después de esas jornadas tuve claro que teníamos que plantear en este parlamento por encima

sobre la investigación del sistema actual la necesidad perentoria de cambiar el sistema de comedores actual y que es

objetivo de país a día de hoy cambiar el sistema de comedores no es una necesidad para el gobierno

podemos mantenernos en el rifirrafe permanente sin necesidad de cambiar nada cambiar este sistema es una necesidad para nuestros hijos e hijas

es una necesidad para las familias de este país es una necesidad para nuestros centros educativos y para nuestra economía y también es una necesidad

para los niños y niñas de este país porque se merecen el mejor

no es el mejor posible se merecen un sistema saludable un sistema saludable que permita prevenir la obesidad infantil y en las jornadas estas de alimentación saludable salieron los datos por ejemplo de que en japón por ley cada escuela tiene que tener cocina

infantil del tres coma siete por ciento mientras que en euskadi si no me corrige la consejera estamos en un once por ciento tres veces más tres veces más

una gráfica donde se ve la evolución de la calidad nutricional de los menús a medida que pasa el tiempo

después de media hora la calidad nutricional ha caído pero es que después de dos horas ha caído a la mitad nuestros escolares comen los menús seis horas después no dos seis horas después y hemos basado un sistema en el catering

educador que eduque en buenas costumbres y también en buenos hábitos alimenticios y vuelvo a recalcar aquí la estrategia para la prevención de la obesidad infantil que también ha presentado nuestro gobierno el departamento de salud

y no solamente tiene que ser un sistema mejor para nuestros hijos e hijas también para las familias

que puedan saber con total transparencia de dónde vienen sus cuotas qué parte de la financiación del sistema aportan y sobre todo

la relación calidad precio es buena o incluso mejor y también tiene que ser un sistema mejor para las escuelas porque allí tenemos a unos trabajadores y trabajadoras que cuidan de los comedores que cuidan de los patios y que están sometidos a unas condiciones de trabajo cuanto menos mejorables

en un espacio el comedor que es y estos son estudios oficiales la principal fuente

dijo una de las comparecientes que vinieron también a la comisión de educación decía la motivación de la plantilla es un factor esencial en la calidad final del servicio deberíamos de ser conscientes de eso de esa cuestión

pero como digo no solamente las familias no solamente los niños y niñas no solamente las escuelas nuestra economía también agradecería un mejor sistema de comedores escolares

estamos importando el noventa por ciento de los alimentos que consumimos en este país

se enfrenta a graves dificultades a la hora de exportar sus productos situación cuanto menos incierta y al hilo de un debate que tendremos posiblemente próximamente sobre los aranceles impuestos por trump tendríamos que plantearnos nuestros productos agroalimentarios en qué medida

no voy a hacer la broma de decir cuánto vino se consume en nuestras escuelas pero sí podría

venido de otros sitios por ejemplo pero hoy además es el día mundial contra cambio climático y tenemos que decir que este país desde hace varios meses está en emergencia climática

no solamente estamos importando gran parte de los alimentos sino que los traemos de la otra parte del mundo

se consumen en cuanto a pescado se consume panga venido de asia perca venida de áfrica y tilapia venida de sudamérica esto es lo que están

en muchas ocasiones nuestros escolares y además se enfrentan a que con ese tipo de alimentación están peor nutridos

guztion artean gure sistema hobetzeko termino citando de nuevo

gozo de alimentación saludable y la presencia que tuvimos en la comisión de educación del asesor del gobierno de escocia en temas alimentarios presentó el programa escocés good food nation

toda una política alimentaria toda una declaración de intenciones con inversiones millónarias en alimentación escolar con inversiones millónarias para conseguir que la alimentación en sus centros escolares fuera más saludable con límites al azúcar a la carne roja con incremento de frutas y vegetales con restricciones en la publicidad

una política que les ha llevado a invertir más de cuatro millónes de libras en alimentación escolar pero que en palabras de su propio asesor les ha traído unos retornos una amortización de tres libras por cada libra en forma control de la obesidad en forma de lucha contra el cambio climático y en forma de impulso de su economía que ha pasado a tener un cincuenta y tres por ciento de proveedores locales

cada comunidad se debe reconocer en su modelo escolar

es a día de hoy un país con una cultura gastronómica propia que genera orgullo en todas las personas que formamos parte de este país de esta sociedad

por qué no aunar ambas virtudes por qué no aunarlas en un sistema de comedores que nos genere orgullo

por nuestra tradición gastronómica por nuestra cultura gastronómica y que además este arraigado

un sistema de comedores que nos dé la certeza de que estamos haciendo

y lo imposible porque nuestros hijos e hijas tengan el mejor sistema de comedores que este país les puede ofrecer eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

gracias presidenta consejeras señorías buenos días

en primer lugar hay que agradecerle al señor becerra su moción

y su disposición al acuerdo y el tratar de encauzar una cuestión importante para todos y para esta cámara y desde luego para la sociedad

nuestros niños y niñas en las escuelas y en los colegios en las ikastolas de euskadi

la comisión de investigación de los comedores escolares

sus frutos esta enmienda de transacción es buena muestra de ello valida aspectos importantes de los trabajos de esa comisión de investigación el gobierno con esta firma también ha reconocido la necesidad de mejoras y la necesidad de cambios y eso es importante

el pasado día pero hoy es importante aunque sea de esta manera a través de una enmienda de transacción en relación con la mejora con las nuevas formas de gestionar los comedores escolares y eso figuraba además en las

muy importante nosotros poníamos en valor del dictamen de la comisión de investigación pero había que concretar lo que el gobierno debe hacer y

del parlamento vasco sigue siendo importante yo echaba de menos echo de menos una referencia más concreta en el texto acordado

negado en banda en relación con esta cuestión pero lo importante no es eso lo importante es

al gobierno en un corto plazo a hacer determinadas cuestiones aunque todos sabemos lo que hay detrás de esta iniciativa y los efectos a los que responde los efectos regeneradores

acertado y ha acertado el señor becerra trayendo esta moción y gestionando su texto como decía responde a las recomendaciones de la comisión de investigación que voy a recordar

subsanar a fin de evitar futuros casos de concertación y reparto del mercado entre empresas así como mejorar la confianza el precio del servicio que se ofrece a las familias decía también en lo que respecta a la contratación de los testimonios escuchados podemos concluir que tanto los requisitos de homologación de las empresas como los procedimientos de contratación del servicio han puesto una barrera de entrada a las empresas que por su tamaño o experiencia

y por ende la posibilidad de una mayor calidad a un menor precio y decía también todo ello hay que añadir se ha referido el señor becerra

importante el relevante papel que el servicio de comedor juega en el ámbito escolar y que ha de caracterizarse por aunar una doble función la educativa

y la de prestación de un servicio público además decía sin olvidar también los compromisos que el gobierno vasco ha asumido con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas en lo que tiene que ser en la contratación pública responsable bueno y a partir de ahí

descentralizada del servicio sobre el precio del servicio sobre elaboración de pliegos sobre los anuncios previos de licitación sobre la división de lotes sobre los tribunales de contratación sobre el control a posteriori de los contratos

las que va a tener que trabajar desde luego el gobierno nosotros a la vista de la iniciativa

hablado de adoptar en el plazo inmediato las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones y además hablábamos de tres meses para un informe de medidas y actuaciones en ese sentido cuestiones técnicas y jurídicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha de un sistema de gestión de comedores

lo que hacemos es entre todos los grupos en este caso es

precisa de cambios y mejoras en sus procedimientos de adjudicación transparencia control bueno eso

ha quedado bien claro habla de un máximo de cuatro meses en relación con un proceso de información para contrastar todo ello todas esas necesidades

en otras ocasiones en el parlamento veremos por donde van estas solicitudes pero en cualquier caso hay están y se recuerdan

y en colaboración con los agentes de la comunidad educativa se culmine ese análisis de los diferentes modelos de gestión descentralizada de los comedores escolares y a partir de ahí

ese plazo de cuatro meses acordar una nueva redacción de normativa

en relación con esta cuestión yo creo que es un acuerdo importante desde luego agradecemos a todos la disposición y votaremos a favor eskerrik asko barrio jauna

antes de nada voy a tener que agradecer no solamente a nuestro compañero

que no solamente han estado participando sino empujando peleando debatiendo muchas veces incluso enfadándose entonces hoy yo creo que es un buen acuerdo simplemente porque es

de pelea y de trabajo también a las trabajadoras cómo no

si necesitamos resultados diferentes las cosas que tendremos que hacer efectivamente tendrán que ser diferentes no valen las mismas recetas de siempre guzti hau dela eta ikastetxe bakoitzak

han pasado veinte años de un modelo de comedores que ya está caducado veinte años que han dado para mucho efectivamente pero sobre todo porque ha habido un cambio sociológico importante

la igualdad a los niños o niñas transportadas incluso hoy se ha convertido el jantoki en un espacio absolutamente de asistencia asistencialista se puede decir

donde la calidad del propio servicio y tanto de los espacios como de la comida se pone en duda o se ha puesto en duda una y otra vez hoy es el momento de pasar página

eta egokiak izan beharko dituzte gaur eztabaidatzen dugun ereduan lo decíamos la semana pasada pero lo hemos estado diciendo durante los últimos meses y años hoy después de la comisión de investigación abrimos por fin una ventana después de cerrar una puerta y hoy podemos decir que es un buen día podemos decir que es inicio de la siguiente etapa y décimos eso porque euskal herria bildu deja sus propuestas sus enmiendas de adición al margen deja pelos en la gatera pero queremos aportar queremos entrar en este acuerdo porque nos parece que es un paso importante a pesar de que podría haber sido un pelín más ambicioso que este modelo

y que hay que escuchar a la comunidad escolar la teoría la sabemos como decía mi compañero becerra toda la teoría de los jantokis nos la sabemos

desde luego los comedores pueden y además son de hecho una oportunidad deben ser además una oportunidad en beneficio no solo de aquellos que comen todos los días en el comedor

también de sus trabajadoras y no nos olvidemos que los comedores pueden ser una oportunidad enorme para crear el famoso ya desarrollo territorial ese desarrollo que tanto nos gusta llamar pero que al final no es más que un desarrollo económico

por eso el acuerdo que llegamos hoy aquí entendemos que es importante para crear o para empezar la casa por los cimientos no por el tejado como estaba hasta ahora vamos a hacer una casa

porque hay que promover un modelo diverso un modelo participativo educativo y un modelo además en colaboración con las administraciones locales ahí creemos que se abre una oportunidad enorme de trabajo también tengo que hacer un reconocimiento

en euskal herria bildu y también un reconocimiento

remarcar pero que han estado ahí durante los últimos años peleando yo diría que de una manera valiente contra corriente eso es así

que tenemos ahí encima de la mesa lo que se ha hecho lo que se ha hecho bien lo que se ha hecho mal y tenemos que hacer una lectura unas experiencias a valorar

las han pedido hoy la verdad es que creo que es un momento de felicitación para todos los grupos creemos que es un buen acuerdo de nada nos vale aprobar en esta casa mociones que luego no se vayan a cumplir así que nos volvemos a poner el objetivo de seguir vigilándola en el primer punto entendemos que las mejoras en la adjudicación

pero bueno la segunda hablamos de los pliegos de condiciones que condicionarán quién y quién no puede trabajar en esos comedores absolutamente necesario

que las comunidades que lo necesiten que lo soliciten que lo tengan garantizado el tema de la apertura de la gestión descentralizada y con la colaboración de las administraciones locales nos parece necesaria y además una buena oportunidad de trabajo y desde luego las condiciones laborales de las trabajadoras que aquí también se ha nombrado y que muchas veces se pone en duda y no están donde deberían

creemos que es por el bien de quienes lo usan todos los días de niños y niñas pero también de la sociedad en general

es una herramienta que el gobierno encima debería aprovecharla porque va a ser eficaz

y desde luego creo que lo he dicho más veces entendemos que un pacto de país en este tema

no puede ser ni siquiera discutible en esa desde luego nos vamos a encontrar bukatzeko

hoy se demuestra que quien sigue la consigue muchas veces enfrente de lo que el gobierno hace o no hace eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta hoy debatimos una moción de elkarrekin podemos relativa a los cambios que precisa el actual modelo de gestión de comedores escolares venimos debatiendo a lo largo de más de un año y escuchando en comisión tanto a las empresas vinculadas

la gestión de comedores escolares el último debate lo tuvimos el pasado diez de octubre cuando debatimos el dictamen final de la comisión de investigación de la adjudicación del servicio de comedores escolares

debate todos los grupos sacamos nuestras propias conclusiones y debatir sobre los cambios que precisa el actual modelo de gestión de comedores es en cierto modo el cierre de este periodo el cierre de una etapa a la que analizamos todos los sucesos o supuestos que tras la comisión de investigación se han dado

o buscar otros modelos o alternativas de gestión con el fin de mejorar este sistema entre todos porque desde que empezó la comisión de investigación solamente había

cambios en el sistema por eso digo que este periodo sería la culminación de una etapa que dé comienzo a otra en la que gracias a una denuncia allá por el dos mil trece nos sirva al menos para mejorar y hacer un sistema

y no solo entre los que estamos aquí junto con el departamento de educación sino que se haga también como dice la enmienda junto con la comunidad educativa con su apoyo y colaboración

porque como bien sabemos existen centros educativos bien es cierto que hasta hoy los menos pero los hay en los que tiene una gestión descentralizada

en los que mantuvieron sus propias cocinas con sus cocineros y siendo ellos mismos los encargados de comprar los productos nos pueden servir como ejemplo

lo que ha funcionado hasta el momento lo que no y las dificultades que pueda tener

a aquellos centros que opten por no tener una gestión directa con el fin de que dichos centros puedan decidir qué tipo de servicio de comedor quieren tener

en los debates de la comisión de investigación es evidente

que hay que hacer cambios en el sistema es necesario que el sistema se modernice se actualice y además siempre que sea para incluir mejoras y una de ellas

tanto en los procedimientos de adjudicación como la transparencia y el control

diseñó unos nuevos pliegos encaminados a favorecer la competencia a eliminar las barreras de entrada y se blindaron los pliegos ante una posible concertación de empresas

de los precios definitivos que se establecían además la señora celaá en su comparecencia también explicó los cambios que introdujo para hacer una modificación del servicio de adjudicación de comedores escolares que seguramente hubieran funcionado si no hubieran sido recurridos y no pudieran ponerse en aplicación con esto quiero decir que se han hecho cosas que se ha trabajo y que se apostó por introducir modificaciones y mejoras en el sistema con el fin de mejorarlo

un nivel óptimo por ello entendemos que hay que regular otros modelos de gestión pero atendiendo y también sobre todo a las familias sin que exista perjuicio económico para ellas

aun así no podemos olvidarnos ni tampoco omitir

aunque es mejorable en algunos aspectos como hemos dicho ha sido muy bueno una cosa es la adjudicación a las empresas que es el tema que estamos tratando hasta ahora y otro es el servicio propiamente dicho el servicio real que se ha prestado a los centros públicos educativos

exceptuando el perjuicio a la administración no ha existido perjuicio económico para las familias

de los alumnos y alumnas algo que parece que se da por supuesto y se pasa por encima pero me parece que es fundamental para la tranquilidad

de intoxicación alimentaria ni un solo caso se ha dado en ningún centro público como de este modo por desgracia no se puede decir lo mismo en los centros concertados o en las ikastolas por ello lo que tenemos claro los socialistas es que independientemente del servicio por el que opte cada centro escolar que sea un servicio directo

la seguridad alimentaria es uno de los elementos que tiene que estar absolutamente garantizada debemos atender a la importancia que supone este servicio para toda la sociedad vasca y para el correcto funcionamiento por el que debemos velar que además garantiza una conciliación familiar real en ese aspecto los criterios y principios que debe regir cualquier servicio de comedor deben ser la seguridad alimentaria

el correcto servicio y unas buenas condiciones laborales para los trabajadores además de incorporar un mayor número de cautelas y ser más riguroso y exigente a la hora de desarrollar

y por supuesto asegurar ese servicio todos los días en todos los centros escolares en definitiva me alegro mucho de que hayamos podido alcanzar un acuerdo unánime en este punto

de un tema como es el servicio de comedores que afecta directamente a las familias de la comunidad autónoma y a la educación en su conjunto hombre yo no voy a ser tan optimista

a los problemas del planeta yo voy a ser un poco más humilde pero me parece que tiene que tener cuatro rasgos fundamentales transparente eficaz sano

bueno es innegable que este sistema ha cumplido su papel como decía el señor pastor es cierto que todos los sistemas todas las formas de gobernanza tienen su momento álgido y tiene su momento de cambio y de renovación un sistema que da noventa y tres mil menús

a través de una evolución y que como dice la resolución que firmamos todos los grupos necesita cambios y mejoras pero también es cierto que

como modelo único ha llegado a donde podía llegar hay ahora unas demandas sociales que exigen otros tipos de modelos más descentralizados más participativos más sostenibles por qué no y más saludables y yo creo que a esas demandas sociales hay que hay que darles también una solución

sus cuestiones controvertidas y más que controvertidas diría yo y tampoco se puede negar eso y está ahí coincido con la señora lopez de arroyabe pues que este acuerdo podría haber sido más ambicioso

le hubiera gustado aquí nos encontramos con varias cuestiones eh bildu tiene un modelo de comedores escolares

es al gobierno a quien le corresponde negociar y acordar con todos los agentes educativos el modelo que va a tener el país no podemos suplantarlo en ese sentido

en cuanto a la definición de las características de este modelo pero creo que le corresponde al gobierno hacerlo nos basta con tener una hoja de ruta nos basta con decirle al gobierno por dónde tienen que ir los pasos qué pasos tienen que dar eta zailtasunak

izateko yo lo que sí creo es que este sí es el momento de cambiar

un año hablando de esta cuestión el debate sobre el modelo de comedores viene de más atrás viene por lo menos del dos mil dieciséis e incluso antes

este es el momento porque como ha dicho la señora berasaluze la mesa de trabajo que se hizo con los agentes sociales llegó a su término porque este año vence la vigencia

tiene el gobierno y porque también hemos superado la fase de la comisión de investigación que ha como ha dicho el señor barrio ha trasladado sus recomendaciones que creo que

lo que no creo es que esto se cierre aquí señor pastor lo que sí creo es que la labor de los grupos de oposición es seguir controlando que el gobierno actúe correctamente

o si seguimos enfangados en esta cuestión no me gustaría finalizar sin agradecer y es cierto que lo he olvidado en mi primera intervención el papel de los agentes sociales

agentes sociales como justicia alimentaria o incluso sindicatos como lab pasaron de la protesta

y creo que fueron los primeros agentes que dieron ese paso podían haberse quedado en la protesta y sin embargo fueron más allá en ese sentido fueron ambiciosos fueron propositivos

esa palabra la ambición pero no la ambición mal entendida de resolver un problema como sea sino la ambición de conseguir el mejor modelo escolar para nuestros hijos e hijas porque si bien usted señor pastor

es cierto que en algunos ayudan ayudan a mejorar la economía ayudan en cuanto a su sostenibilidad pero tenemos que ser conscientes de la importancia de la alimentación en cuanto a poner el foco en los niños y niñas

su desarrollo intelectual su salud e incluso

de mi intervención nos jugamos también que nuestros hijos e hijas que los jóvenes de este país piensen alimentario en términos de una pizza de cuatro quesos o lo piensen en términos de una

y eso es lo que nos estamos jugando ahora mismo no solamente el futuro de nuestros hijos e hijas y de su salud sino también el modo en el que vemos

que el partido popular traiga a este parlamento iniciativas en relación a la familia en este caso una moción consecuencia de interpelación

del fracaso de las políticas del gobierno vasco en relación a las políticas

en la anterior replanteamos al gobierno y a la consejera que lamento que no esté en un debate entiendo que para ella

tiene que ser interesante me imagino que los consejeros y el señor erkoreka que también me está siguiendo muy atentamente luego se lo trasladará todo minuciosamente

la anterior interpelación hablábamos de si era

un fracaso de un gobierno que ha llegado tarde y mal un gobierno que ha tenido una falta absoluta de liderazgo en esta cuestión de ambición

del país vasco y la propia realidad y la problemática de las familias vascas le ha pasado

para el partido popular como decía se ha plasmado en numerosas iniciativas yo voy a ir directamente a la moción para explicar el contenido de la misma y centrarme en aquellos puntos que hemos considerado más relevantes y que

hay una coincidencia en algunos de ellos con otros grupos aunque como se

de la moción en su conjunto sobre el conjunto de la misma no ha sido posible llegar a un acuerdo pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos hay coincidencia entre todos los grupos entonces bueno que espero también

a la hora de la votación también todos podamos ser flexibles para que

de exigencia hacia el gobierno vasco en una materia en la que claramente las cosas no se han hecho nada bien

en donde las partidas relativas a las ayudas

por nacimiento y en las ayudas para la conciliación

en las enmiendas que han sido presentadas por el partido popular y algunas de ellas aceptadas fruto de la negociación presupuestaria y tenemos que lamentar que el gobierno vasco haya incumplido estos compromisos de destinar el dinero que además estaba consignado a las familias vascas por su propia por la propia incapacidad de aprobar los instrumentos necesarios para poder poner en marcha

esas ayudas y por lo tanto ejecutar las cantidades que estaban asignadas pero no solo esto sino que también el gobierno

aprobación de los instrumentos necesarios que han configurado el marco para impulsar medidas concretas de apoyo a las familias vascas me estoy refiriendo al cuarto plan de familia el tercero acabó su vigencia en el dos mil quince

medidas que han llegado tarde a día de hoy la única medida efectiva en materia de ayudas a las familias que se ha aprobado ha sido la de incrementar una anualidad por el segundo hijo de dos a tres años casualidad señora consejera y ahora aprovecho que se haya incorporado al debate para decirle que cada vez que este grupo presenta alguna

concreta sobre aspectos que el gobierno en teoría consideraba cruciales pero que luego en la práctica obviamente no se ha demostrado así por su propia

en medidas concretas y efectivas en este caso para las familias vascas pues

acelera la tramitación del decreto de las excedencias voluntarias

que obviamente ese decreto ha llegado tarde y mal tengo que recordarle que el anuncio usted lo realiza el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho

a propósito también del debate monográfico de las familias le gusta a este gobierno anunciar muchas cosas

esta medida se supone la medida estrella

por hoy es una cuestión que no está resuelta como son la reforma del sistema de protección en euskadi también usted en esta tribuna nos anunció una iniciativa de los grupos pero bueno

y recientemente como digo hace dos días pues aprueba el decreto

para los trabajadores no en el ámbito público que obviamente como el otro día nos decía el señor erkoreka tienen su regulación específica pero tenemos que decir señora consejera que a pesar del tiempo que han empleado en la elaboración de este decreto y a pesar de que también este decreto

del decreto ha sido informado también por los órganos correspondientes y a pesar de muchas de las advertencias

pues ha hecho caso omiso a las mismas una de ellas sí se corrigió pero se corrigió una vez que este tema salió en la prensa

y cuando se quiere establecer unos requisitos adicionales y unas limitaciones a los trabajadores respecto al régimen que está aplicable para los funcionarios unas limitaciones que tenían que ver con que si se tenía una emplea de hogar en casa no se podía acoger a esta excedencia con que si se llevaba al niño a una guardería no se podía coger esa excedencia otra limitación que a nosotros nos parece también un tanto injusta y creo que

muchos padres se puedan acoger a esta medida como puede ser el que los autónomos se vean obligados a contratar una persona quiero decir que obviamente esa medida puede ser absolutamente disuasoria

esta medida de conciliación sea realmente efectiva ustedes han corregido

obviamente ya tenían la advertencia y a pesar de tener la advertencia establecieron ese requisito

de que era difícil distinguir entre cuando uno tenía una empleada de hogar si esa empleada de hogar se dedicaba a sus funciones a atender

a los niños o a labores en la casa también entenderá que establecía una situación muy injusta para aquellos que tienen que los hay y los puede haber obviamente

no contratada legalmente y por lo tanto

a pesar de las sucesivas advertencias de sus informes ustedes han establecido un decreto que es absolutamente discriminatorio y establece discriminaciones muy claras

para los trabajadores en el ámbito privado respecto al régimen que se ha establecido en el ámbito público

no entendemos que haya diferencias también en la duración de esta medida es

dieciocho semanas y si eres trabajador en el sector público

no entendemos esa diferenciación bueno nos decía el otro día el señor erkoreka

que es que el régimen de los funcionarios es distinto al régimen de los trabajadores efectivamente hombre pero lo que tiene que hacer el gobierno es velar

existen discriminaciones entre los trabajadores que están en el

funcionario o eso creo y me parece muy bien pero que al final se trate

gobierno vasco por eso en un punto muy específico de nuestra moción

que puedan existir en cuanto a la regulación de las excedencias por paternidad en el ámbito privado o público creo que esto es un aspecto fundamental

coincidimos el grupo podemos elkarrekin podemos y el grupo eh bildu y por lo tanto creo que aquí es una crítica además compartida

críticas también por parte de distintas entidades y asociaciones

y las cuantías por las ayudas por nacimiento creo también que aquí el gobierno ha incumplido las propias previsiones de sus propios planes en el tercero plan de familia

para las familias ya se establecía el objetivo de converger con europa es que la convergencia ni ha llegado ni se le espera

que es la única que se ha aprobado hasta el martes pasado hasta la fecha de hoy hasta la fecha del martes pasado que era el incremento de esa anualidad de un año por el segundo hijo

en el año dos mil dieciocho por lo tanto esto es una muestra más de cómo se ha tomado

las políticas de familia otro de los puntos que recogemos y que también recogen

creemos que es necesario y hay una necesidad imperiosa de abordar el reto demográfico

y poner en marcha políticas públicas que se pongan en marcha con una financiación presupuestaria que ya esté prevista y también con plazos de ejecución

y en ese sentido también hemos creído conveniente volver a incorporar porque muchas de estas cuestiones son reiterativas

en las empresas y también reconocimiento a aquellas empresas referentes en el ámbito de la conciliación y finalmente en este punto sí hemos coincidido con el partido nacionalista vasco

se configure como una herramienta efectiva de apoyo y acompañamiento en materia de conciliación de las empresas

señora consejera una nueva iniciativa que ha sido necesaria viendo el pésimo balance de este gobierno

está claro que ustedes han erigido en el gobierno de las personas

los problemas de las personas pues desde luego en el ámbito de las familias las políticas de familia todo lo contrario es decir nada más lejos de la realidad creo que ustedes aquí tienen un suspenso claro

un cero pero que han llegado tarde han llegado mal y por eso aparte de criticar que las medidas que se han puesto en marcha son claramente insuficientes

también tenemos que criticar que algunas han llegado tarde y han llegado mal como repito

lo que tiene que ver con la regulación de las excedencias voluntarias en ese sentido les instamos nuevamente a rectificar en otro decreto ya les hemos instado a rectificar esta mañana

tiene que reflexionar en cómo se están haciendo las cosas desde su departamento

grupos pero creo que hay puntos que son coincidentes y en ese sentido apelo

entre las diferentes propuestas besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

buruzko ekimen guztiei pero en esta intervención yo voy a reafirmar lo que ya hemos dicho y por lo tanto ustedes ya conocen lehenik eta behin azalduko dut

que deciden cuidarse en las necesidades básicas pero también en las emocionales

personas que se acompañan en las alegrías y están para afrontar las penas y dificultades personas que están siendo el chaleco salvavidas de protección de un modelo socioeconómico que muy a menudo genera precariedad desigualdad e injusticia

especialmente las de quienes más cuidado necesitan de las que hoy queremos poner en el centro de este debate niñas niños adolescentes adultas mayores de las personas con diversidad funcional y de todas aquellas que de forma transitoria o permanente necesitan especialmente de otras para vivir dignamente familias es en definitiva ese soporte que carga con un peso muy grande que carga con todas las tareas imprescindibles para la reproducción social y el sostenimiento de la vida un grupo de personas que son precisamente por ser sostén de la vida

posible crisis económica que parece que se avecina como de un sistema de protección y de empleo precario y que no están atendiendo a la realidad de una transformación demográfica en este país reto demográfico que se nombra cada diez minutos por parte de las instituciones pero para el cual no hay propuestas serias integrales concretas ni claras por parte de ninguna institución solamente medidas puntuales grandes anuncios y dosis de maquillaje

nos reafirmamos en la necesidad de apoyar a las familias de abordar el reto demográfico y de mejorar la protección social de este país en el que vivimos con una mirada hacia las buenas prácticas y las políticas del norte

y con una mirada de ampliación de cobertura no de recortes señora garrido señores de los grupos que sustentan al gobierno ni aquí ni en ninguna otra institución

laguntza ekonomiak soilik ez dira nahikorik porque además es indispensable abordar de una vez con valentía con cabeza con capacidad para innovar y sobre todo para escuchar a la ciudadanía otras políticas que aseguren que todas las vidas

desarrollan puedan ser plenas puedan ser vidas que merezcan la pena ser vividas que no obliguen a que mujeres madres abuelas hermanas sobrinas o hijas condenen su vida al cuidado vidas que miren a las niñas a los niños a los adolescentes que no les invisibilicen que les protejan y no que les pongan trabas que les pongan facilidades para ser sujetos de derechos que es lo que en teoría reconocemos

pero estrategias que promuevan actuaciones desde diferentes departamentos

estrategias que aborden el reto demográfico en toda la complejidad y que vayan más allá de la actual estrategia de familia que no se ejecuta

que solo han podido hacer entre ustedes bueno y con la patronal

y a las mujeres no se olviden en la esquinita desde elkarrekin podemos creemos que una estrategia de este tipo

de mejorar las condiciones de vida de las familias vascas implica generosidad y valentía implica también que seamos capaces de buscar acuerdos pero eso hoy parece complejo porque la señora garrido nos pone sobre la mesa una propuesta que ella misma

porque no vale señora garrido hacer un discurso defensor de la familia y al mismo tiempo criminalizar a las personas empobrecidas porque las familias también están en situación de pobreza y lo que ustedes haciendo diciendo por ejemplo que hay que obligar a las personas que se cronifican en las ayudas a fichar

a todas ellas compartimos no obstante desde esa actitud generosa que entendemos que hay que tener el contenido de algún punto de su propuesta

pero claro con profundidad con capacidad con contenido no con la propuesta que se aborda en su moción por eso nosotras presentábamos una enmienda en esta línea

compartimos señora garrido también la necesidad de evaluar cómo impactan las leyes en las familias pero qué son las familias y cómo implementamos esto nosotras preferimos evaluar con una perspectiva concreta en la que hay metodología hablar de mujeres

de cómo impactan las personas mayores o en la capacidad de emancipación de la juventud usted parte de una visión un tanto monocromática de lo que es una familia y está obcecada con incrementar unas ayudas que tanto como elkarrekin podemos consideramos perversas porque perpetúan los roles de género compartimos también que no se pueden ni se debe

ciudadanas de primera y de segunda por eso en nuestra enmienda también recogemos el cuarto punto de la suya

por otro lado compartimos totalmente la enmienda de la señora kortajarena y votaremos a favor de ella desde luego que hubiéramos podido trabajar en una transacción que pudiera enriquecer esta propuesta pero para qué

no parece que haya mucha intención de moverse y eso se ve claro cuando se lee la enmienda del pnv y del pse

pero ustedes en serio el señor sainz lanchares director de política familiar y diversidad funcional el cuatro de junio del dos mil diecinueve

en el que dice cito textual el servicio que debe desarrollar el observatorio vasco de las familias en este momento no se realiza

de empleo y asuntos sociales ni por entidades colaboradoras se está trabajando

trescientos nueve barra dos mil diez dos mil diez estamos en dos mil diecinueve no les da ni un poco de rubor poner en su enmienda que el parlamento vasco insta al gobierno a darle un desarrollo preferente a algo que legalmente tendría que estar en marcha desde el año dos mil diez

en serio la segunda es que ustedes no ponen nada que no estén haciendo nada que ya esté mandatado por esta cámara

bien desde las leyes que no paran de incumplir bien desde los planes que parece que no se van a desarrollar nunca para nosotras mejorar la vida de las familias pasa también por cuidar de tener unos servicios públicos dignos y de calidad por tener un sistema de servicios sociales desarrollado y eso ustedes no lo están haciendo desde elkarrekin podemos

generosa que decía antes hemos querido poner una iniciativa partiendo de los consensos y de lo que dice la normativa y es por ello que proponemos que todos los departamentos y todas las instituciones pongan en marcha una estrategia para hacer frente al reto demográfico pero de verdad una que se ejecute

que la estrategia parta de un diagnóstico porque no tendría sentido hacerlo de otra manera pero ese diagnóstico venga a esta cámara y los grupos políticos tengamos capacidad de hacer aportaciones y que recoja también aportaciones de quienes saben de quienes están a pie de calle porque

la ciudadanía siempre va varios pasos por delante de las instituciones que integre el principio de interés superior de la infancia y adolescencia porque eso aún no lo recoge ninguna ley

no lo están cumpliendo pero también que transversalice la perspectiva de género porque la medición del impacto aunque esté en la ley suele

como al gobierno nosotras consideramos que esto es un elemento crucial hay que pensar cómo nos va a afectar a las mujeres pero también

hay que ponerse unas gafas moradas queremos que se evalúe esa estrategia queremos que se mida el impacto sobre los colectivos clave

también instamos a acabar con la distinción entre lo público y lo privado pero con medidas que no sean perversas como le decía hablando también de la igualdad entre mujeres

esta estrategia deberá estar dotada de presupuesto pero no solo para incrementar las ayudas económicas como propone la señora garrido

y para poner en marcha otro tipo de políticas que fomenten la prestación de servicios públicos y de calidad orientados a los cuidados servicios que van a traen consigo la creación de empleo mayores oportunidades de conciliación y de corresponsabilidad mayores en definitiva

que quieran no aquel al que no les queda más remedio que optar para nosotras

hablar de la mejora de la situación de las familias en euskadi es poner una mirada amplia y una visión generosa y desde ahí reitero
que creo que votar a nuestra enmienda es la mejor de las opciones besterik ez eskerrik asko eskerrik asko guanche anderea

tiene unos retos de grandes dimensiones que tienen que ver con elementos que se mencionan y no se mencionan cuando se habla de demografía pero sobre todo tiene que ver con el buen vivir tiene más que ver con el buen vivir que con la natalidad

y con transitar juntas hacia otros modelos más justos y sostenibles

el buen convivir tiene que ver con garantizar y generar condiciones para desarrollar proyectos de vida y de felicidad tiene que ver con proteger y cuidar y es que

un conjunto de medidas para el buen vivir propuestas que surgen desde una perspectiva

interseccional y que buscan un pacto entre generaciones oso proposamen desberdinak horietako asko zuekin adostu genituen

que dice literalmente que dada la centralidad que las prestaciones económicas orientadas a este fin al de la conciliación

como la que ha promovido este gobierno conviene analizar con cierto detalle el impacto y el funcionamiento de las mismas porque dice este diagnóstico este tipo de políticas tienen tanto en su concepción general como en su aplicación concreta una serie de limitaciones que aconsejan una formulación relativamente amplia de las mismas

presidenta hoy debatimos por quinta vez una moción consecuencia de interpelación referente a políticas de apoyo a las familias vascas hemos debatido en mociones anteriores situaciones similares

y dos de noviembre del dos mil diecisiete el quince de febrero del dos mil dieciocho y el siete de febrero del dos mil diecinueve por tanto se ha convertido ya en todo un clásico y el veintiuno de marzo del dos mil dieciocho dedicamos un monográfico

en el pleno de este parlamento donde se acordaron numerosas resoluciones que han sido incluidas con posterioridad dentro del cuarto plan de apoyo a las familias y a la infancia

en apoyo a las familias en nuestra comunidad autónoma de una forma más amplia dentro de dicho pleno fue un plan donde se ha dado en su elaboración una amplia participación en la aprobación del documento definitivo

sería deseable que saliera con el mayor consenso posible porque los réditos de estas estrategias de este tipo de estrategias

global que se mantenga y que no cambie durante mucho tiempo que no sea cortoplacista para conseguir los resultados deseados

y que en esta estrategia se le dé también participación al tercer sector patronales sindicatos y otras organizaciones y también de la importancia de que esa estrategia

cultural y social un cambio dentro de las empresas en definitiva también un cambio de paradigma con anterioridad al monográfico ya se contaba con la estrategia

del dos mil diecisiete se contó con el pacto de familia en enero de dos mil dieciocho y luego

y la infancia por otro lado desde luego la tónica general de todas estas iniciativas señora garrido siempre ha sido por su parte decir no se hace nada no es suficiente lo que se está haciendo lo que sí es una realidad en nuestra comunidad autónoma es que llevamos muchos años efectuando políticas de apoyo a las familias elaborando

la realidad es muy diferente aquí vamos por el cuarto plan somos la comunidad autónoma que invierte más

sesenta y tres coma cinco millónes de euros reconociendo ese derecho como criterios de universalidad y considerándose el derecho subjetivo a las ayudas por nacimiento y adopción se han incrementado las ayudas a las familias en un treinta y tres por ciento

se han dado pasos en aras a sensibilizar a la sociedad y conseguir un cambio cultural en favor de la igualdad y la conciliación y respecto a ayudas a la parentalidad

a la recientemente aprobada por el gobierno de pedro sánchez

a las actualmente establecidas por la seguridad social en materia de permisos de parentalidad que por cierto como he dicho fueron aprobadas por el señor sánchez en febrero de este año no por rajoy aunque estuvo gobernando los siete años anteriores y se va a subvencionar

y el grupo popular sigue poniendo el énfasis en el incremento de las ayudas en el incremento de las cuantías en su propuesta original

en la propuesta de transacción que nos ha planteado esta mañana lo reducía a un punto usted lo reducía simplemente a ayudas a personas

parece que quería recuperar uno de los puntos que planteaba el grupo eh bildu en su enmienda a la totalidad pero se ha quedado hay en el intermedio sin decir ni lo que quería pero bueno

considerábamos que era mejor defender nuestra enmienda a la totalidad que es lo que vamos a hacer y no hemos llegado a una transacción hemos manifestado en varias ocasiones que este debate sobre familias es importante que pase de ser un mero debate sobre las ayudas y pase a ser un debate de derechos eso creo que estamos de acuerdo la gran mayoría los grupos parlamentarios de esta cámara

y que tiene que ver con una realidad demográfica que hay que corregir

y que aunque no volverá a niveles del pasado su tendencia nunca cambiará en la medida que queremos conseguir

que consigan cambiar esa tendencia es necesario llevar a cabo un conjunto de políticas que den respuesta a dos fenómenos la baja tasa de natalidad existente y las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas que ha dado lugar a un crecimiento de la pobreza infantil son mucho más vulnerables las familias con hijos e hijas

la transmisión intergeneracional de las desigualdades lo que pone en cuestión el principio de igualdad de oportunidades

recientemente firmado ha constatado también pese a los esfuerzos realizados en los últimos años que las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas

en los demás países del sur de europa un margen de mejora al menos si se comparan con los que se desarrollan en otros países europeos hay que seguir trabajando para seguir mejorando en estas

por todas las dificultades con las que se encuentran dificultades de tener el tiempo necesario para poder conciliar la vida personal y laboral por la baja corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y

que parte además del reconocimiento del profundo proceso del cambio en el que se encuentran inmersas las estructuras familiares la trayectoria de la vida familiar

familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social por eso nosotros

nuestra enmienda a la totalidad para seguir avanzando para seguir dando pasos en la buena dirección y por eso indicábamos incluíamos

demográfica y se inste al desarrollo preferente

relativo a los observatorios de infancia y familia que ya dijimos nosotros nuestro grupo

que consideráramos que era necesario desarrollar

al sistema de ayudas a las familias con hijos e hijas así como a la sensibilización asesoramiento y reconocimiento a empresas que implementen medidas de conciliación en base a la experiencia kontzilia treinta y por último el parlamento vasco insta

al objeto de hacer llegar a la ciudadanía la información que facilite la toma de decisiones a la hora de conciliar la vida familiar estos tres puntos señora garrido coinciden con algunas de sus propuestas por lo que le invito a apoyarlas para seguir avanzando desde luego

apoyaremos nuestra enmienda a la totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eta iaz hasi genuen bidea pero hete aquí que tras catalogar las políticas de familia de fracaso qué nos propone el partido popular mediante esta iniciativa

en el primer punto propone lo que ya propuso el lehendakari en el pleno de política general en cuanto a reforzar el observatorio de familia e infancia es la actuación ciento once del cuarto plan de familia

se incrementa su presupuesto para el observatorio de infancia en más de un cincuenta por ciento y el de familia

no se trata de financiar excedencias por paternidad propiamente van dirigidas al cónyuge no gestante con el objetivo de promover la igualdad y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado del menor

en cuanto a las ayudas económicas hay tres actuaciones recogidas en el plan señora garrido actuación treinta y cuatro mejora del tratamiento

actuación treinta y cinco creación de un grupo de trabajo interinstitucional para analizar las posibilidades

y actuación treinta y seis mejora gradual de las prestaciones económicas

para su punto seis el plan de familias contempla la actuación dieciocho reorientación de las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia

con el decreto del pasado martes se mejora un treinta por ciento las ayudas por excedencia a las familias numerosas monoparentales o monomarentales con algún miembro en situación de dependencia o discapacidad o con alguna persona víctima de violencia de género

al objeto de mejorar la cobertura de las ayudas a familiares en situación de especial necesidad con esto asimismo con el decreto publicado el martes se mejora otro treinta por ciento

de proyectos piloto y planes de conciliación de la vida laboral familiar y personal en las empresas

o la actuación veinticinco reconocer el papel de las empresas líderes y referentes en la aplicación de medidas de conciliación y corresponsabilidad mediante un sistema de premios y reconocimientos

o la veintiséis impulsos de sistemas de acreditación y certificación de las medidas de conciliación

se ha contratado recientemente el asesoramiento sobre conciliación y gestión de la web

ya ves señora garrido un fracaso donde los fracasados van por delante de las propuestas que usted propone para dar un giro a estas políticas creo realmente que es usted la que va tarde y mal

en relación a la enmienda de elkarrekin podemos creemos que en el punto uno queda superada con la de momento propuesta

de política general

del lehendakari creo que supera con creces su propuesta señora guanche creo que mediante el decreto que se publicó anteayer el programa kontzilia treinta y actuaciones

abordar con determinación o uno se puede instalar sistemáticamente en la autocomplacencia que es lo que hace este

entiendo que hoy no sea un buen día para esta consejera en particular después del resultado de la votación sobre los centros residenciales en las que se le insta a revisar el decreto reconozco que no será tampoco un buen día para la consejera y en conjunto para el gobierno vasco cuando hoy conociendo los resultados de la epa mirábamos las cifras de destrucción de empleo en el conjunto de españa

de esta legislatura y en concreto del departamento de empleo y políticas sociales porque en este caso estamos hablando de un ámbito concreto pero creo que esto ya es extensible al conjunto

fundamentales del departamento de empleo y políticas sociales por lo tanto sigan ustedes así y veremos el balance que tienen cuando acabe

que esta parlamentaria en su moción ha copiado algunas de las cuestiones que se contemplan en el

y algunas de las que ha dicho el lehendakari pero es que viendo que este gobierno algunas de las cuestiones que ha dicho el lehendakari no se ha puesto en marcha han considerado oportuno

cuando había una previsión muy concreta en relación de incremento de anualidades y de las cuantías de las ayudas para las familias con hijos y la única

que es el incremento de esa anualidad en un año por el segundo hijo de dos a tres años

y llegó en verano del dos mil dieciocho por lo tanto no me diga las previsiones de sus planes porque ya vemos en qué quedan las

al impulso de las iniciativas de los grupos de la oposición en esta cámara claro el tema de las excedencias claro sí el decreto se aprueba martes día veintidós esta moción fue registrada el día quince y bueno

este gobierno en algunas de las propuestas que ha contemplado en su decreto

de las medidas que ya proponía el partido popular hace tiempo claro el tema de las excedencias resulta que si en esta comunidad autónoma eres funcionario o eres mujer te va muy bien eso sí como seas hombre

lo tienes fatal porque ya digo que si eres mujer o eres funcionario

y trabajas en el ámbito privado pues me parece que hacemos un pan con unas tortas porque estamos hablando de corresponsabilidad y conciliación y luego

que trabajan en el ámbito privado que tienen unas condiciones de conciliación y de corresponsabilidad a la vista está peores que en el ámbito público y encima hacemos normativas y promovemos normativas que incrementamos esas diferencias pues viva la conciliación y la corresponsabilidad porque desde luego creo que el objetivo que persigue este gobierno claramente no se cumple claro me decía la señora

le agradezco que me reconozca mi perseverancia en este tema igual que en otros

hecho una propuesta alternativa y ni se han molestado quiero decir que a la vista está de lo que ha llegado

es que muchas de ellas este gobierno no se ha dignado

más allá de que en ese pleno monográfico se nos anunció la famosa es por el progenitor no gestante el cien por ciento de la base de cotización

ha llegado cuando ha llegado y como he dicho antes tarde y mal

y señora guanche pues igual no compartimos el fondo pues sí creo que

pues tenemos posiciones diferentes y vamos al fondo pero en cuestiones concretas que usted ha plasmado en su iniciativa en su enmienda y en la mía como propuesta original

distinciones en el ámbito privado y en el ámbito público ustedes también hablan

y creo que en este caso el gobierno con el decreto que han aprobado se han quedado bastante a medias

no ha conseguido el objetivo que se perseguía ya veremos además los efectos de ese

o si con esas limitaciones que a día de hoy se siguen manteniendo a pesar de que se reconoció por parte del gobierno que se podía hacer una revisión de las mismas pues no se han revisado las mismas solo se ha revisado la limitación del requisito de las empleadas de hogar veremos a ver los efectos de este decreto si va a ser disuasorio o no y si en definitiva va a ser efectivo pero mucho me temo que desde luego no se va a cumplir el objetivo previsto yo les animo a que miren con atención la propuesta del partido popular y bueno pues puedan votar algunas de las

partes señora sánchez yo lo siento pero le voy a enmendar algo porque invertir mucho no siempre es invertir bien y usted no está siendo del todo honesta con la cantidad de millónes que ha nombrado

porque en el informe de impacto de género de los presupuestos tanto

consiguieron aprobar emakunde dice que de las ayudas que existen a la conciliación solo hay dos que se pueden entender como ayudas que contribuyen a la corresponsabilidad y la conciliación tenemos las ayudas

que emakunde en su informe de impacto de género considera perversa

tenemos las ayudas para la contratación a trabajadoras de cuidados que esas sí

y también este decreto que lleva vendido no sé cuantos meses pero que por fin parece que se acaba de aprobar pero luego tenemos otras ayudas económicas para familias con hijos e hijas que son ayudas de corte claramente demográficos no son ayudas que contribuyan a la conciliación y a la corresponsabilidad

no me va a dar gato por liebre entonces invertir bien no siempre es invertir mejor entonces habrá que evaluar qué es lo que estamos haciendo y por qué todos los años todas esas bolsas con dinero

en el momento en el que se cogen la excedencia la gente no las pide porque es que a lo mejor del aire no estamos acostumbrados a comer

señor urrutia una afirmación del lehendakari que no sabemos lo que contiene supera mi iniciativa porque usted lo dice supera al resto de puntos porque ya se hacen los decretos los venden siete veces antes de que existan

porque no tienen quien haga el trabajo pero da igual seguimos impulsándolos preferentemente hay un derecho reconocido a los servicios sociales pero la mitad de los que reconoce la ley que deberían de existir

hay un derecho reconocido a la vivienda pero hay un montón de gente que tiene reconocido el derecho que no acceden ni a la prestación

a los que la gente no puede acceder pero no pasa nada ustedes todo

se sobra yo sí que quiero para terminar este debate aclarar algo

que es algo fundamental que se tiene que hablar en esta cámara y que no puede salir solo de la cabeza del lehendakari o de algunas iluminadas o de pricewaterhousecoopers o vete a saber de quién

y que se ha quedado parece ser en un cambio de palabritas porque el paradigma en el que estamos sigue siendo el mismo para nosotras

de reto demográfico es hablar de feminismo es abordar la realidad de una sociedad envejecida que necesita cuidados que no se le están prestando como la gente los necesita

que tiene trabajo y es pobre es hablar de gente que no tiene quién la cuide

que no accede a los servicios públicos que existen porque lo que hay no les está sirviendo y eso hay que evaluarlo

en euskadi hay niñas y niños que viven en situación de pobreza y que se ven condenadas a reproducir esa pobreza porque no pueden romper con la espiral de la pobreza intergeneracional y no pueden porque los servicios públicos

o no se les está dando las oportunidades para que rompan con eso porque ni las prestaciones de garantía de ingresos

y eso es algo que tenemos que abordar y yo insisto creo que es un tema lo suficientemente importante como para que lo hagamos entre todas con medidas valientes con una mirada amplia mucho diálogo señor urrutia cuando usted quiera nos sentamos y revisamos lo que sí se hace y lo que no se hace

intervención evidentemente proponer medidas para avanzar es constructivo y desde luego en esa línea tenemos que seguir

para cambiar las sinergias que existen en este momento en el ámbito de tasa de natalidad y en toda la estructura de políticas de a las familias y en ello estamos por eso he dicho que íbamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad no nos gustaba la enmienda a la totalidad de bildu donde considerábamos que tampoco se pedían cosas nuevas porque en uno de sus puntos

el que se cumplan las recomendaciones aprobadas en el monográfico hombre evidentemente están aprobadas están para para ser cumplidas

a las familias y luego en uno de los puntos ponía en valor el actual decreto de conciliación que es bueno

mucho más también pedían la transferencia de la seguridad social ya la hemos debatido aquí en este parlamento no aportaba tampoco nada nuevo

podemos pedía una estrategia de trabajo interdepartamental nosotros ya recogemos en nuestra enmienda a la totalidad

demográfica y además recogíamos otra serie de puntos por eso he dicho que nosotros vamos a apoyar esta enmienda a la totalidad que hace referencia a puntos concretos para seguir avanzando en la buena dirección

andrea señora garrido yo creo que

y ya estamos en el cuarto tardó pero llegó tardó pero llegó

todo lo que usted proponía está recogido en este plan está calendarizado y se está

en la medida en la que se puede materializar en el tiempo de vigencia de este plan

de que usted registró el día quince la iniciativa y que el decreto viene del día veintidós hombre no estará pensando

porque usted registró no no no me haga así por que léase

le dijo estará para el día veintidós léaselo léaselo ha hablado usted de

que al decreto y si mi información no es incorrecta

excepto por una asociación o sea por todos excepto por una asociación y

qué balance tendrá este departamento a final de legislatura bueno

diferirán bastante señora guanche claro que hay una propuesta sobre estrategia demográfica que la hizo el lehendakari y además

los temas que habría que tocar y tengo aquí

dos mil treinta en materia demográfica que además de las iniciativas en marcha incorpore una batería de nuevas actuaciones tractoras

a tal efecto se creará un grupo de trabajo interdepartamental planteará las siguientes líneas de acción avanzar en la implantación de medidas que promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado

mejorar las ayudas a la natalidad mediante prestaciones económicas y ventajas fiscales plan de vivienda especialmente pensado para jóvenes

socialización de la aportación de la migración y la necesidad de medios en materia de permisos de residencia trabajo cualificación profesional y apoyo a la integración plan de concienciación social para poner en valor la corresponsabilidad el esfuerzo personal y familiar el compromiso con las generaciones futuras

de un proyecto de sociedad cohesionada su calado es de gran profundidad y alcance estratégico usted yo recuerdo que lo que venía a decir en el primer punto de su enmienda era básicamente a

que esta propuesta que es una propuesta hecha en el debate de política general y en ese debate puede tener

que superaba el punto primero de su enmienda la estrategia del pacto de familias y la estrategia

usted ha hablado de que se pactan con la patronal que yo recuerde esto el pacto de familias tuvo

y luego se hizo además un pacto interinstitucional con los tres niveles institucionales luego yo creo que hay veces que no se puede meter todo en el discurso de cada cual es decir

pero en este caso los acuerdos se tomaron

en otros ámbitos qué duda cabe que con la patronal también habrá que contar para la conciliación de la vida laboral y personal también con la patronal con los sindicatos con los distintos agentes sociales

pero claro yo tenía el texto de la señora garrido y le puedo asegurar que el primer texto que tuve en el ordenador era uno que le hubiera gustado a usted mucho que decía siga avanzando siga desarrollando

prefería hacerlo más corto y fijarnos

pero es que la señora garrido va por detrás entonces yo realmente tenía dos opciones esa